ematen diona como ya adelantaba en euskera

en lugar de repetir todas las actuaciones en relación con todos las áreas de trabajo

aludir someramente algunas de las cuestiones más significativas que

al disfrute de los derechos ciudadanos me referiré pues a algunos temas que considero de especial relevancia problemas que afectan a niños niñas y adolescentes

a la inclusión social de las personas desfavorecidas a una problemática específica que ha adquirido

aludiré también a la cuestión del refugio y la acogida haré una breve reflexión en torno a la política penitenciaria y mencionaré por último las iniciativas desplegadas por la institución del ararteko en el ámbito europeo e internacional

el número de expedientes del ararteko en los que se tiene constancia de la presencia de niños niñas y adolescentes

de cuatrocientos setenta y ocho más o menos el dieciséis por ciento del total de las quejas presentadas ante la institución esta institución

en relación con la infancia un enfoque fundado esencialmente en respeto de los derechos de los niños niñas y adolescentes

como saben el interés superior del menor y su derecho a ser escuchado son la clave de bóveda del cambio de paradigma que introdujo

es decir la consideración del niño o niña como titular como sujeto de derechos sin embargo esta consideración

cuando se adoptan decisiones que afectan a niños niñas y adolescentes

los relativos a la infancia en desprotección donde se viene observando una cada vez mayor atención a la salvaguarda de estos derechos no obstante en general subsiste un desconocimiento preocupante

que no se aplican o no se incorporan las normativas sectoriales tampoco en consecuencia se realizan esfuerzos suficientes a nuestro juicio de capacitación de los y las profesionales que trabajan e interactúan con los niños para que les presten a estos derechos la atención adecuada

metió una observación general sobre el interés superior del menor según la cual se trata de un concepto triple en el que como además del principio de interpretación cobra especial relevancia

lo que exige valorar en cada decisión que vaya a afectar a un niño niña o adolescente o a un grupo de ellos cuál va a ser el impacto de la decisión en sus vidas

sencilla de exponer pero que admito es difícil de aplicar es lo que intentamos analizar desde la oficina de infancia y adolescencia del ararteko en cada caso

uno de los ámbitos que resulta relevante y urgente es precisamente el de las políticas de garantía de ingresos

un reciente análisis de indicadores de privación

en la encuesta de pobreza y desigualdades sociales de euskadi de dos mil dieciséis destacaba el significativo impacto de la pobreza y la precariedad en niños y niñas y adolescentes vascas muestra que las carencias asociadas a la

y otras formas de ausencia de bienestar incluso las más graves no están totalmente erradicadas entre la población menor incluso en un territorio como el vasco con un sistema de garantía de ingresos comparable a los más desarrollados de la unión europea

considerando al conjunto de menores en euskadi entre uno y quince años un diez coma cuatro por ciento sufre todavía ciertos problemas de privación

por ciento si se consideran en exclusiva las formas más graves de privación por ejemplo el acceso a comida proteínica cada día acceso diario a fruta verduras

por todo esto y una vez más el ararteko hace suyas las palabras del autor de este estudio al que me estoy refiriendo cuando señala que la sociedad necesita tomar conciencia

para la igualdad de oportunidades de las nuevas generaciones de niños niñas y adolescentes estamos hablando ciertamente

me referiré seguidamente a la cuestión que mencionaba

lamentablemente la violencia machista ha sufrido un repunte

ha dejado dolorosas secuelas dos mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas ana belén residente en álava y aparecida asesinada en miranda de ebro

de sestao además de estos datos hay que añadir otras dos mujeres guipuzcoanas

la sociedad vasca ha demostrado que no tolera ningún tipo de violencia contra las mujeres

y a tantas otras desconocidas y saludar la firmeza de la reacción social vasca contra la violencia de género

por un amplio consenso en dos mil diecisiete se han anunciado reformas y nuevas medidas en el plan estatal para eliminar esta lacra desgraciadamente aún no se ha

sin embargo euskadi debe avanzar con premura y decisión en este ámbito ejerciendo todas sus competencias independientemente del avance de las reformas propuestas en el ámbito estatal el nuevo marco que genera este pacto así como las prioridades europeas

en este contexto se hace especialmente necesario renovar el compromiso de todas las instituciones firmantes en el acuerdo interinstitucional vigente en euskadi

así como a los requerimientos europeos e internacionales dotándolo de bases más sólidas en favor de la indispensable y coordinación institucional contra la violencia de género

otras instituciones vascas coordinadas por emakunde

en la evaluación de los servicios y medidas de atención a mujeres que han sufrido violencia machista hay que establecer

y plantear mejoras de los servicios públicos que en este ámbito se prestan en euskadi con todo resulta esencial aunar esfuerzos para establecer en las agendas políticas vascas la prioridad de acometer las reformas o iniciativas necesarias orientadas a asegurar a intensificar la efectiva atención apoyo y protección a las mujeres y niños víctimas en los ámbitos por supuesto propios de intervención de nuestras administraciones singularmente en materia de servicios sociales educación sanidad protección policial y coordinación con la justicia otro apartado relativo a la cuestión de la igualdad es la relativa a la brecha económica entre hombres y mujeres que se ha convertido en una prioridad a escala europea e internacional

el índice global de brecha de género de dos mil diecisiete que fue publicado por el foro económico mundial

habrá que esperar al menos un siglo así la paridad salarial entre hombres y mujeres no se alcanzaría

no sé si estaremos allí para verlo no vamos por buen camino

se ha ampliado por primera vez en la última década el ararteko considera que el país vasco podemos y debemos aspirar a una

de mayor contundencia articulando si fuera preciso medidas legales específicamente encaminadas a este fin para reducir y acabar con la injusta y persistente brecha económica

convergiendo también para ello con los objetivos europeos sentados como prioritarios en la estrategia europea

que desarrolla la dimensión de género de la estrategia europea dos mil veinte

entre esas prioridades destaca la de incrementar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo la de ampliar la de su independencia económica reducir dicha brecha salarial

combatiendo de este modo la mayor prevalencia de la pobreza entre las mujeres y promoviendo la igualdad en la toma de decisiones estas prioridades deberían servir para asentar en la sociedad vasca

económica también debo referirme en este apartado a las cuestiones de acoso por razón de género y el acoso sexual el acoso sexual no es inofensivo y tiene enormes costes

se trata de una manifestación más de la ideología patriarcal y una expresión de la violencia machista existe actualmente un amplio consenso tanto en el ámbito internacional como en las instituciones europeas

y con el estigma social que ha llevado a las víctimas a las mujeres a silenciar esta forma de violencia

se impliquen plenamente en el esfuerzo de comprometer a hombres a chicos

a jóvenes en la prevención de la violencia contra las mujeres la igualdad de género es una responsabilidad que compete sin excepción a todas las personas

pero que puede además derivar en consecuencias trágicas que son desgraciadamente todavía frecuentes

en ese sentido convendría que se promovieran medidas específicas para fijar criterios

en cualquier ámbito laboral educativo cultural o social canales efectivos de expresión para interponer esta clase de denuncias

con protocolos claros y fomentar una educación en valores que permite identificar de modo consensuado

y el acoso sexual entrando ya en la cuestión de la inclusión social

afectan especialmente a mujeres pero a mujeres en quienes concurren además otros factores de

el origen especial mención merecen las familias

una expresión que está emergiendo familias formadas por mujeres solas extranjeras

debe incluir no solo decididas políticas de género sino políticas de apoyo a los grupos más vulnerables también debe mencionarse

la necesidad de medidas para su promoción y participación social y económica responde a compromisos éticos y jurídicos

de conformidad con la estrategia europea para la inclusión social de la población gitana

la manera en la que el rechazo social que padece la población gitana se erige en una dificultad añadida para las posibilidades de su inclusión y progreso social

las ventajas de disponer de un sistema de prestaciones sociales de contenido económico especialmente durante la reciente crisis

muchas familias han podido vivir con dignidad y evitar caer en procesos de exclusión graves

de ayudas sociales el departamento de empleo y políticas sociales ha llevado a cabo un trabajo riguroso de análisis recogida y tratamiento de información que permite concluir

que los casos detectados apenas sí alcanzan al uno por ciento de las revisiones realizadas la gestión de las prestaciones de la renta de garantía de ingresos

que realiza lanbide desde el año dos mil once tuvo un inicio complejo pleno de dificultades y desajustes pero

que progresivamente ha ido mejorando su funcionamiento el análisis de las miles de quejas que el ararteko ha tramitado en relación con las prestaciones sociales

sobre la gestión de estas prestaciones desde la perspectiva de la defensa de los derechos de las personas vulnerables

que esta institución ha dirigido al departamento de empleo y políticas sociales más específicamente debo destacar en este terreno

la necesaria motivación de las resoluciones la audiencia previa a cualquier decisión limitativa de derechos la necesidad de una información adecuada

la importancia del registro de la documentación presentada o la publicación y actualización de los criterios que se aplican en la tramitación de estas ayudas

coordinación entre lanbide los servicios sociales y el departamento de vivienda

asimismo deseo señalar la ineludible necesidad de prever la formación del personal que atiende y gestiona estas prestaciones

el disponer de una normativa clara y transparente en materia de requisitos y obligaciones que deben cumplir las personas para ser perceptoras de prestaciones económicas

y proporcionadas a la pérdida de requisitos o al incumplimiento de ciertas obligaciones prestando especial atención al interés superior del menor

a lo largo de estos años esta institución ha analizado numerosas quejas

entre la conducta reprochada a la persona y la respuesta sancionatoria debe también mejorar también por el volumen amplio de reclamaciones que se presentan ante el ararteko los procedimientos de reclamación de prestaciones

la situación de personas en situación de exclusión social grave sin ingresos es un motivo que preocupa

por ello debo insistir en la dificultad de acceso a la vivienda que sufren determinadas personas

de alquiler como por los requisitos y garantías que se exigen a ciertos demandantes de vivienda

obstaculizan sus posibilidades de un acceso normalizado a la vivienda por otra parte las dificultades para acreditar un domicilio están

para acreditar el cumplimiento de los requisitos de acceso a la rgi

y pobreza extrema que no pueden acceder a las prestaciones económicas

este parlamento debatirá pronto la mejora del sistema de prestaciones económicas en este empeño saben que

bultzatuz en el ámbito de la educación merece señalarse el amplio número de quejas me estoy refiriendo a casi quinientos

o estando cursando enseñanzas de educación de personas adultas han obtenido o están a disposición de obtener el título de graduado en educación secundaria obligatoria

es el cambio introducido en las instituciones correspondientes a la admisión en matrícula de los centros públicos

ciclos formativos de formación profesional en euskadi a tenor de este cambio se otorga preferencia para el acceso a ciclos formativos de grado medio dentro de la cuota reservado a graduados en educación secundaria

obligatoria en opinión de los promotores de las quejas este cambio de ordenamiento implica un agravio comparativo

ya con anterioridad la admisión de algunas quejas puntuales

hizo que la institución solicitara la colaboración del departamento entonces departamento de educación política lingüística y universidades

diferenciado entre los mismos titulados a efectos de acceso

aquella actuación permitió conocer que la razón para tal decisión era la voluntad de dar prioridad al alumnado que concluye la etapa de escolarización de secundaria obligatoria con la finalidad de que continúen formándose en estudios superiores

todo ello atendiendo al interés superior del menor

el abandono escolar a menos de un diez por ciento sin embargo a la vista de las numerosísimas quejas formuladas en dos mil diecisiete

la posible proporcionalidad de la medida ya que el elevado número de quejas recibidas puede ser indicativo quizás de unas consecuencias perjudiciales

debo señalar que los responsables del departamento de educación se han mostrado dispuestos a seguir la petición del ararteko

un análisis estudio de esta cuestión a medio plazo en relación con las personas

y la protección a las personas refugiadas no puede obviar la necesidad de articular fórmulas legales que permitan la entrada en europa

es preciso abandonar la ficción según la cual las fronteras pueden llegar a ser impermeables a la entrada de personas

para desincentivar a muchas personas cuya primera opción hubiera sido la de seguir el procedimiento legal abocándolas a recurrir a peligrosas aventuras

e irregulares la gestión pública de los movimientos migratorios permitiría hacer políticas territoriales de acogida que eviten los temores actuales de la población generados por la improvisación también permitiría a los países de origen de donde proceden las solicitudes y analizar otras medidas

para lograr avanzar en un programa complementario de acogida a personas refugiadas

a los compromisos derivados de derecho humanitario internacional el ararteko valora positivamente estos esfuerzos que

con otros defensores del estado y de otros países europeos y del mediterráneo promoviendo acuerdos y manteniendo relaciones y reuniones con el gobierno vasco

las organizaciones sociales vascas han permanecido muy activas en la defensa de los derechos humanos de los refugiados

de las personas que buscan protección internacional y promueve la búsqueda de soluciones hay que decir que entre las personas defensoras de los derechos humanos hay una preocupación creciente por la criminalización de las actuaciones en defensa de los derechos humanos de los demandantes de asilo o migrantes irregulares este riesgo es elevado en algunos países de europa

y cuando se trata de un delito de tráfico de personas la directiva del consejo

ser revisada los casos de helena maleno

son suficientemente elocuentes y han provocado actuaciones del ararteko ante sus homólogos países no podemos olvidar finalmente que la sociedad vasca tiene un reto importante el de prestar suficiente atención a la acogida de las personas solicitantes de refugio pero también a su ulterior integración entre nosotros sin discriminación

y los proyectos pilotos en curso las personas en prisión representan uno de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad por ello la reclamación de la transferencia penitenciaria reiterada por el gobierno vasco

para que sea consciente de que la cárcel no es una entidad lejana y ajena sino una realidad cuya responsabilidad recae sobre la sociedad vasca en su conjunto

es el signo que permite evaluar el estado de civilización de una sociedad en este sentido si bien no cabe duda de que la transferencia favorecerá

la conciliación colectiva es preciso insistir en la necesidad de que la labor de reinserción que ya se está llevando a cabo en euskadi se articule mediante un sistema integral y coherente se trata de una labor ubicada en espacios socio sanitarios socio jurídicos y socio laborales diversos lo que hace necesario una planificación y coordinación

empleo asuntos sociales seguridad sanidad justicia paz y convivencia

armonicen procedimientos pongan en común esfuerzos e iniciativas deben arbitrarse convenios sin compromisos plurianuales para el desarrollo de programas

de igualdad y sin otra limitación que la derivada de su propia condena al haber normalizado los servicios sociales educativos sanitarios y de promoción laboral que organizan y gestionan

las recomendaciones que al respecto viene formulando el ararteko cobran pleno sentido en todo caso en el marco de un modelo penitenciario propio un sistema integral de ejecución penal que no aumente la marginación y cronifique los factores que llevan a delinquir a juicio de esta defensoría

la universidad del país vasco inspirándose en las reglas penitenciarias y europeas

no quisiera finalizar este punto sin realizar un apunte sobre política penitenciaria esta estaba determinada y condicionada en las últimas décadas por la lucha antiterrorista

criminal facilita una interpretación de la ley que como esta institución siempre ha recomendado resulte más acorde con la finalidad rehabilitadora de las penas posibilitando la aplicación a presos y presas de criterios de reinserción

debemos por lo tanto reiterar la conveniencia de modificar en ese sentido la política penitenciaria en materias como el traslado a cárceles del país vasco o próximas a nuestra comunidad autónoma

o excarcelación de quienes padecen enfermedades graves o incurables

discretamente eso sí el ararteko ante cuantas instancias sociales e institucionales ha tenido ocasión

para que el final del terrorismo y su deslegitimación social ética y política favorezca un modelo de convivencia basado en los respetos de los principios democráticos y de los derechos de todas las personas

miembros del gobierno parlamentarias y parlamentarios hemos estudiado con gran interés como lo hacemos todos los años el informe del ararteko del dos mil diecisiete y quiero decir que el ararteko

figura fundamental en nuestra arquitectura institucional y por qué lo es porque nosotros los legisladores

desde luego no pueden ser leyes ad hominem es una cosa que está absolutamente fuera de lugar son leyes que miran el interés general y los gobiernos

y siempre como decíamos nunca ad hominem sino siempre con vistas al interés general pero el ararteko es un puente

y haciendo las leyes y gobernando con un deseo de una convivencia justa y armónica

que las leyes no contemplan o no recogen porque es imposible las casuísticas son tantas como ciudadanos hay

es el ararteko el que viene aquí y en el que en sus informes pone y ojos individualizados a esas personas cuya casuística no entra dentro de las normativas no entra dentro de las leyes y unas normativas y unas leyes que se han diseñado como decíamos para propiciar una convivencia justa y armónica para esas personas en concreto se convierten en barreras y esto sucede claro

por eso creemos que el ararteko es una pieza fundamental de nuestro entramado y se nos puede preguntar y se nos debe preguntar cuál es nuestra opinión

dos mil diecisiete vamos a ver el ararteko intervino

instancias promovidas por los ciudadanos si lo dividimos entre los trescientos sesenta y cinco días del año

y de esas iniciativas nueve mil quinientos ochenta y dos fueron quejas y aquí viene nuestra primera

algo negativa porque tenemos que decir que de las actuaciones que dictaminó como incorrectas el ararteko fueron resueltas

pero no fueron resueltas el doce coma treinta y nueve por ciento

no estamos hablando de que las tenían que resolver ciudadanos

entidades privadas no no estamos hablando de las administraciones y es difícil entender por qué las administraciones no resuelven el doce coma treinta y nueve por ciento de los

en los que el ararteko les ha recomendado hacer algo es difícil entenderlo por supuesto el ararteko

dentro de muchas áreas pero las que nosotros destacamos son las áreas de inclusión social que tienen el treinta y uno coma cinco por ciento de los casos

de educación que tienen el veintidós coma sesenta y nueve por ciento de los casos el ararteko también nos ayuda a ver tanto a los legisladores como al ejecutivo dónde están las lagunas de ineficacia más

al ararteko nos señala qué zonas son aquellas menos satisfactorias en otras administraciones nos ha preocupado también

se refieran a la upv también nos da esa pista el ararteko si no tuviéramos el informe esto serían datos desperdigados por las distintas consejerías a los que no tendríamos un acceso de forma tan clara entonces sabemos que en la upv tenemos algún problema

no satisface al nivel de otras áreas a los ciudadanos y luego se nos preguntará nuestra valoración del ararteko pues bueno nosotros somos portavoces de los ciudadanos pero en este caso no es que seamos ya portavoces solo sino somos transmisores

los cuales consideran que la actuación del ararteko ha sido buena en un treinta y cinco coma cincuenta y dos por ciento y muy buena

estamos hablando de cerca de un setenta por ciento de los ciudadanos

sino de aquellos ciudadanos que han tenido un problema concreto y que han ido con una actitud probablemente dolida probablemente angustiada es decir ciudadanos complejos de satisfacer bueno pues prácticamente el setenta por ciento de ellos consideran que la actuación del ararteko ha sido buena o muy buena el veredicto nosotros como legisladores es lo que tenemos que transmitir porque aquí no necesitan portavoces los ciudadanos ya han hablado y luego con respecto de cómo ha resultado la gestión del ararteko

muy positiva creen que es el cuarenta y uno coma ocho por ciento y positiva el veintisiete coma ocho por ciento es decir volvemos a estar en cifras cercanas al setenta por ciento qué opinión nos merece la labor del ararteko durante el año dos mil diecisiete

los ciudadanos lo aprueban con un notable alto y eso es lo que nosotros adoptamos como postura sí que hace el ararteko incidente en algunas cosas que tenemos que mejorar y como no hay tiempo las voy a leer rápidamente

utilizado como forma de denegar una petición el ararteko nos dice que no podemos usar

porque utilizando este tema no tenemos necesidad de razonar por qué

eso nos parece fundamental arreglar lo del silencio administrativo negativo

nos habla en las viviendas de quejas en los defectos constructivos de las vpo en las que se inhibe el departamento y dice que meramente observa y levanta acta cuando por cierto siempre hay fianzas que se pueden ejecutar para

si la vpo que se entrega tiene algún tipo de deficiencia

para poderla arreglar y el ararteko se queja de que

que no que sencillamente ellos levantan acta inspeccionan y como me queda poco tiempo quiero volver a hacer

en que el ararteko nos pone ojos y caras de las personas que se encuentran en una situación desfavorecida por unas leyes

y a favorecer la convivencia y mire es conmovedor

por eso por lo que digo porque nos pone ojos una mujer que tiene treinta y ocho años y seis meses y va a pedir un tratamiento de fertilidad a la sanidad pública

se la deniegan y por qué se la deniegan dicen porque el tope son los cuarenta años

hay tanta lista de espera que cuando te llegue la vez

cuarenta años se dan cuenta de la necesidad del ararteko una mujer treinta y ocho con seis años dice bah todavía tengo año y medio voy y porque la lista de espera es tan larga que para cuando te toque a ti

que es la edad tope para esto es necesario el ararteko

una persona mayor que va a un centro de día y mientras asiste a ese centro de día se va deteriorando se va deteriorando

que ya no es capaz de seguir las actividades del centro de día

en el centro de día que le recoge a las noches que ese mayor está en su entorno familiar con sus familiares que durante el día va al centro de día

le echan porque en el periodo que ha estado se ha ido deteriorando y que ya no participa en las actividades

pone ojos y caras a aquellas personas cuya casuística la normativa no protege sino que al contrario perjudica
muchas gracias eskerrik asko bengoechea andrea

ojos que decía la señora bengoechea

algunas personas de esta cámara de observadores internacionales que hoy seguro que lo están pasando un poco más mal

de parlamentarios volviendo al tema es verdad y lo han dicho muchos y

estamos hablando de la radiografía que hace en su informe de la situación social de las personas del estado que las mismas ocupan en la sociedad y de las circunstancias que lo llevan a tener situaciones desiguales injustas perjudiciales o discriminatorias la falta de igualdad entre hombres y mujeres entre los de aquí y las de allá o los que somos de aquí y las que vienen de allá los que tienen

los que creen o tienen fe en una sola deidad los que tienen varias los que no tienen dioses pero tienen fe y los que no tenemos ni una cosa ni la otra también los que no saben si creen o no

la igualdad y la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios públicos

la ciudadanía vasca y hacerlo en unas condiciones óptimas

de derechos y servicios que hasta ahora venimos y tenemos establecidos

el grupo socialista en la comisión son los que en este caso también destacaremos en el pleno los que se refieren a la exclusión social a las quejas y reclamaciones relativas a la exclusión social que creo que el

y que se derivan de la falta de igualdad entre las personas y se centran básicamente

complementaria de vivienda en todos ellos se refieren a

y en la mayoría según se informó en comisión se habían podido resolver los mismos en este momento hay un proceso de reflexión para la reforma no solo de la rgi me consta sino también más adelante el propio servicio de lanbide en una puesta al día para su mejora y garantía

y en ellos creo que podrá también incluirse todos estos informes del ararteko tanto los ordinarios como extraordinarios que en su mayoría se refieren efectivamente

primeras en las quejas o reclamaciones pero nosotros también nos referimos a otro tema en concreto que también se ha citado

educación y en particular a las realizadas por los centros de adultos sobre la falta de plazas para la matricula en formación profesional ocasionada

sean cubiertas por alumnos y alumnas que finalizan la secundaria y que optan por esta salida como opción para la formación profesional pero la preocupación del grupo socialista no solo que no haya plazas

coincidir con aquellas que sufren desempleo de larga duración

la formación profesional en un país como el nuestro líder en la innovación

en todo lo que son soluciones relacionadas por la formación profesional se ofrezca esta

formativa a aquellas personas que tienen fracaso escolar o se hace para evitar el abandono escolar nos ha parecido

educativas no solo ya que no haya plazas para aquellas personas más mayores sino que se ofrezca a los y las jóvenes

y precisamente para evitar el abandono escolar cuando es precisamente

de potenciar en todo el estado y en europa también pero especialmente en nuestro país sí ha hablado también de igualdad no voy a

esa eliminación me referiré efectivamente y resumiendo a que el ararteko

sabemos la feminización de la pobreza y la feminización de la violencia

y mucho más gravosos en aquellas que no lo son pero me referiré especialmente a la violencia

machista como lo hice en la comisión creo que hay que recuperar el impulso que hubo en otros tiempos en el reforzamiento y la lucha contra la violencia machista porque es necesario porque

al lado lo tenemos todos los días porque todos los días sabemos que no solo es matar a una mujer sino que se la menosprecia se la acosa

o se la cosifica con lo cual puede dar a lugar al final a la violencia contra la misma

en el ámbito judicial también para la violencia contra las mujeres sabemos que hay un cambio de rumbo esperamos que esa formación de jueces pero no podemos

de un texto normativo que complemente que coadyuve a todas las medidas que se hacen a nivel estatal y europeo

contra la violencia de género en este caso somos una de las pocas comunidades o al menos de las que no tiene ley contra la violencia nosotros entendemos que esa ley es necesaria está en el acuerdo de gobierno entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista y dada la situación en la que se encuentra

cuanto más pronto esté encima de la mesa mejor haremos nuestro trabajo las instituciones vascas y las fuerzas políticas vascas

medidas que se adopten en otros ámbitos institucionales y sociales

también me referiré por último a la violencia contra los niños y niñas ha hablado de la pobreza infantil

pobrezas o diferencias que a nosotros y a nosotras a las socialistas especialmente nos

de la brecha digital que empezó especialmente durante los años

y que la formación y la educación a través del mundo digital no está garantizado por igual para todos los niños y niñas de euskadi y acabaré con el abuso

estamos preocupadas por la situación no solo del abuso sexual sabemos que la invisibilidad del mismo

garantía sabemos por el ararteko que se está preparando un protocolo de actuación que vaya desde el centro de salud pasando por la escuela las familias y la propia justicia pero nos preocupa especialmente esta última en ese sentido quiero recordar que la comisión europea

para conocer si se aplica la legislación de forma garantista para la protección de los menores ello

la comisión además dio crédito a las quejas sobre aplicación

contra las madres y sobre la falta de credibilidad que algunos tribunales otorgan al testimonio de niños y niñas

eso ocurre también aquí y nosotras debemos de dar una respuesta para proteger a los niños y a las niñas al menos dentro del sistema judicial

en sus diferentes etapas de madurez la prueba

y el niño no puede ser utilizado nunca cuando se esté investigando un abuso dentro de las peleas de la guardia y custodia entre otras cosas porque el niño

con la persona que estaba abusando de ella

las debidas garantías en el proceso judicial a mí me parece muy grave

del sistema y yo sí pediría especialmente sé que se van a hacer unas jornadas por parte del ararteko

que se investiguen cuales son los huecos y las ausencias del proceso judicial que no proteja a los niños y a las niñas
y que se tomen las medidas cuanto antes porque día que perdemos día que un niño está siendo abusado sin ninguna consecuencia muchas gracias eskerrik asko romero

arartekoa ezinbesteko erakundea da y es por ello que no solo agradecemos su trabajo sino que esperamos que este se vea fortalecido y que todas

le ponga buenos oídos a los que nos plantea en su informe en los extraordinarios y en el que hoy se presenta no podemos empezar este discurso sin llamar la atención a los muy preocupantes datos

cincuenta por ciento de las actuaciones que realizan tienen que ver con la precariedad económica hay un aumento de la infantilización de la pobreza de las quejas relacionadas que afectan a la infancia

casi quinientos hay una vulneración habitual del principio de interés superior de niñas y niños y una tremenda desigualdad en la atención a esas niñas y niños por parte de nuestras instituciones en euskadi

un porcentaje alto de llamadas de atención por parte del ararteko al deber de informar que tiene este gobierno un porcentaje interesante de quejas no aceptadas y no resueltas por parte del gobierno vasco un porcentaje muy alto de quejas que tienen que ver con la desproporción con la que actúa esta administración sobre la ciudadanía

lanbide sobre las personas perceptoras de renta de garantía de ingresos y es que el conjunto de este informe desvela que tenemos mucho por hacer un año más y como yo no tengo que ser tan políticamente correcta como el señor ararteko voy a bajar a lo concreto

salud y educación una pena que ninguna de las personas responsables estén aquí para escucharlo mil quejas en total en solo estos tres departamentos más de cuatrocientos expedientes de actuaciones incorrectas con un cincuenta por ciento de las resoluciones no aceptadas

a lanbide cual protagonista indiscutible con sus ochocientos quejas que suponen el cuarenta por ciento del total de este informe el cuarenta

solo se responde favorablemente al trece por ciento y el sesenta por ciento no son aceptadas sesenta

lanbide en cuanto al deber de informar ha sido el organismo estrella de este informe

doscientos veintidós no existe ningún otro departamento que se le acerque

si entendemos también este informe como una evaluación es la que peor se porta porque le dicen que no a la defensoría del pueblo más de la mitad de las ocasiones que esta le interpela y eso perdóneme la franqueza

estaría colorada y no tomando café a mí desde luego todo esto me da mucho que pensar en materia de salud no nos quedamos cortas independientemente de lo que den de sí

tienen ciento veintidós quejas ya entiendo que al lado de lanbide lo del departamento de salud es casi sobresaliente pero igualmente hay que

pero también hay deberes para el verano el departamento de salud en cuanto a las listas de espera y en concreto en algunas especialidades y respecto de algunas intervenciones

más transparencia atención personalizada a quienes están en esas listas de espera y reasignación de recursos a las listas con más demora hay que dar aire a las consultas de rehabilitación

de las personas presas que no cuentan ni con atención especializada ni con medios para complementar su diagnóstico

o a su situación de salud a pesar de lo dicho en este informe año

creemos que esto es urgente porque los procesos de participación en negociación sindical no agotan el proceso democrático

le permitiría al departamento reducir gran parte de las quejas y disfunciones que tiene

totalmente discriminatoria que ha sufrido el alumnado de graduado de educación secundaria

que el que se obtiene en un instituto y todo este alumnado se ha quedado en la cola este hecho automáticamente convierte el título ges obtenido en el centro epa en un titulo de segunda categoría

porque esto nos lleva a crear una bolsa de exclusión y nos gustaría que lo escuchase nosotras lo que necesitamos es más cohesión no más exclusión le vamos a dar el voto de confianza de que tras el verano nos presente ese estudio que le comprometió al señor lezertua para demostrarnos que esa discriminación no es tal

porque si no podemos llegar a pensar que entre la concentración de alumnado de familias de bajo índice socio económico en algunas escuelas el no acceso de personas adultas a la formación profesional en igualdad de condiciones en lugar de una educación pública y de calidad que es lo que necesitamos lo que diseña

segregadoras no vamos a pensar eso como tampoco vamos a pensar que sea intencionada la omisión de cumplimiento de la resolución de noviembre de dos mil diecisiete

en la determinación de los precios públicos por último y sobre este apartado nos llama la atención la queja relativa a la protección de datos del alumnado y ya sé que dirán ustedes que aquí está de nuevo la pesada

así es la vida mientras tengamos instituciones que no atienden a la protección de la gente y en este momento a la protección de los datos seguiremos en materia de trabajo empleo y seguridad social se evidencia que lanbide no cumple sus funciones en cuanto a la incorporación al mercado laboral ordinario de las personas demuestra la necesidad de que los servicios de intermediación han de mejorar y han de cumplir su objetivo y todo esto

con el acuerdo marco entre el gobierno y confebask lejos de resolverlo

en materia de vivienda hablamos junto con el ararteko del parque ínfimo y de la necesidad

en materia de igualdad también hay tarea para el verano pero esta vez y es lo más preocupante es a repartir en todos los niveles institucionales

medios públicos que no admiten a mujeres seguimos sin medidas específicas

tienen canales para realizar denuncias respecto al acoso sexual es preciso un código ético para el personal de la administración y una profunda educación que acabe con la lacra de la discriminación de las mujeres para terminar y porque hoy nos toca ser cortas no queremos terminar sin hablar de la situación en euskadi de las personas migrantes y refugiadas porque ayer fue el día internacional de las personas refugiadas sí pero sobre todo porque ayer hoy y mañana

y los grandes ofrecimientos que no llegan a concretarse en las medidas necesarias

o como las que todos los días viven las personas que no están entrando en los dispositivos de acogida son intolerables salgan o no en la prensa

dirigidas a luchar contra la discriminación medidas que no llegan o no solucionan a pesar de las recomendaciones que se repiten a año medidas que aunque estén detrás de una manifiesta voluntad política se ven agravadas por una cuestión que determina este informe y que hoy no ha sido nombrada todavía y es que dice que desde determinados servicios públicos en euskadi se discrimina a las personas por su origen y no hay ni recursos para evitarlo

cuestiones a las que no ayudan señoras y señores de este gobierno las campañas de criminalización de la pobreza y que determinan desde luego que este gobierno tiene mucha tarea esperamos movimientos y los esperamos pronto porque no podemos permitirnos si queremos ser una sociedad decente

egin dira eta gai sozialetatik ehuneko laurogeia tal y como queda reflejado

es muy alto de la totalidad de las solicitudes planteadas y enviadas se han resuelto el noventa y tres por ciento

diversas realizadas teniendo en cuenta que las peticiones del ararteko no tienen un carácter vinculante estos datos

él mismo reconoce que la relación con la administración es fluida efectiva y resolutiva en general el aumento de la receptividad de las administraciones es constante

la credibilidad del ararteko unida a la buena disposición de la administración lleva a mejorar en la atención el trabajo entre ambos es eficaz

son cuatrocientos noventa y dos los expedientes que afectan a niños niñas y adolescentes un dieciséis coma treinta y siete por ciento del total de los expedientes presentados